tras la lectura del informe de la cora me vinieron a la cabeza dos ideas la primera que el gobierno de españa

de ver la viga en el propio porque no parece muy lógico que diagnostique que las duplicidades en euskadi sean cien y que en españa cero y a nosotros al menos no se nos escapa que las mayores duplicidades en euskadi se dan con respecto a la administración del estado y sobre todo que muchas duplicidades

porque evidentemente se da una duplicidad y además de manual donde siendo nuestra la competencia no se ha producido la transferencia estamos de acuerdo en que tenemos que simplificar y reducir las estructuras para hacer de la nuestra

en este sentido ustedes presentaron el plan de racionalización y por la información que usted aportó la semana pasada en sede parlamentaria

efectivas y se están cumpliendo con los objetivos del plan por lo tanto no es admisible que desde madrid se pretenda una reforma pero eso sí

porque aquí hemos hecho nuestros deberes y los hemos hecho entre todos basta recordar algunos de los datos que aportó el lehendakari la semana pasada

el riesgo de pobreza en euskadi es del diez coma cinco mientras que en españa es del veinte coma cuatro la deuda media por habitante en euskadi es cuatrocientos euros menos que la de los municipios españoles sin caer en la autocomplacencia porque todo en esta vida es mejorable pero los datos ahí están y son más que evidentes por lo tanto que en el informe de la cora se proponga la supresión

y una relevancia tal como el tribunal vasco de cuentas públicas o el ararteko o la agencia vasca de protección de datos la verdad que nos parece un auténtico despropósito

mayores controles en la gestión del dinero público y resulta que ahora desde madrid se nos recomienda suprimir este órgano pues bien señor consejero fruto de todas estas reflexiones y de nuestra preocupación le formulamos la siguiente pregunta piensa adoptar el gobierno vasco alguna de las

baitigu eta hori horrela dela ikusten baitugu egunean egunean porque efectivamente la ofensiva recentralizadora impulsada desde los poderes centrales del estado está siendo

algún título competencial lo hacen en términos tan expansivos y tan invasivos que acaban anulando literalmente las competencias sectoriales autonómicas correspondientes

una regulación autonómica que la tabla de los años ochenta que era posible en los años ochenta y en el marco de la cual miles de ciudadanos vascos suscribieron contactos con ese tipo de entidades de previsión

eso sí el estado inmediatamente copió la normativa vasca la incorporó a su ordenamiento jurídico pero dejando claro que ahora la competencia ya no es autonómica sino del estado lo estamos viendo ahora clarísimamente también con el asunto de la ertzaintza la ope de la ertzaintza una vez más se quiere desconocer el singularísimo régimen que la ertzaintza ha tenido siempre en virtud de su entronque

y lo que se nos dice es que se tiene que ajustar rigurosamente a las normas básicas del estado en el ámbito de la función pública como si fuera la policía local

claro cuando no tiene título competencial de invocar pues todavía estamos mucho peor porque entonces utiliza la fórmula a la que usted ha hecho referencia propone la supresión de órganos y entidades creados por las comunidades autónomas en el ejercicio legítimo de sus competencias

acusándolas de duplicidad las duplicidades siempre las generan las comunidades autónomas nunca el estado o lo que es peor no adoptan ninguna medida en ese sentido pero

con las notificaciones edictales que antiguamente se podían hacer a través de cualquier boletín y ahora solamente se pueden hacer válidamente a través del boletín oficial del estado esto desde hace un mes es así esto hace un mes cuando

ahora lo repito esto no lo hemos visto ni en el franquismo

agresivo e invasivo bien este es el panorama en el que nos encontramos centralismo a mansalva pero también mucho cinismo fíjense porque algunas medidas de la cora aprobada por el consejo de ministros

autonómicos consultivos porque todos decían que eran reiterativos repetitivos y duplicidades del consejo de estado que se servía por sí solo para responder a todos

ahora que ha dejado el gobierno se ha refugiado precisamente en un consejo consultivo autonómico el de madrid

este es no solamente el centrilismo sino también el cinismo con el que están actuando el gobierno central en esta materia yo le puedo asegurar

respecta vamos a resistirnos rotundamente a la aceptación de cualquier medida que suponga la más mínima erosión del autogobierno vasco vamos a ser firmes y rotundos eskerrik asko

in extremis en diciembre mientras tanto los ayuntamientos que pudieron hicieron frente también como pudieron a los vecinos que acudieron a sus puertas a solicitar esa ayuda

arcas municipales y consiguieron rascar cinco coma tres millónes de euros con los que afrontar esas necesidades asumieron casi la cuarta parte del total del gasto público en estas atenciones por eso le pregunto si su gobierno este año

si asume ya las carencias de muchos ciudadanos sus emergencias y tal y como le ha propuesto mi grupo en una iniciativa va a decidir ampliar y dar prioridad

señora mendia voy a intentar responderle tomando lo que usted misma en la justificación plantea y también en su intervención ha querido

y las ayudas de emergencia social yo creo que es conveniente en el día de hoy también insistir en que no son lo mismo y que es muy importante aclararlo cuantas veces sean necesario la renta de garantía de ingresos la renta de garantía de ingresos es un derecho subjetivo

toda persona que se encuentra en situación de necesidad tiene derecho a la ayuda esta ayuda no está sujeta a ningún tipo de restricción presupuestaria en el gobierno vasco

están cubiertos por lo tanto sin embargo las ayudas de emergencia social la ayuda de emergencia social sí es una ayuda complementaria no es un derecho subjetivo

el criterio del gobierno tiene tres componentes prioridad renta de garantía de ingresos también prioridad en las ayudas de emergencia asocial pero realismo y claridad

de emergencia social a pesar de que no son un derecho subjetivo y que nacieron con una vocación puntual son una prioridad y volveremos a incrementar su dotación siempre que tengamos capacidad presupuestaria para hacerlo eso sí lo haremos con realismo

por el momento reducir otras partidas presupuestarias y no precisamente las de los servicios esenciales de las políticas públicas sociales eskerrik asko

es un criterio que sirve para atender a lo urgente y además de las personas que cobran la renta de garantía de ingresos que hemos llegado a unos niveles altísimos en euskadi debido

y el mantenimiento en esos niveles de búsqueda de empleo con dificultades también tenemos un grupo de personas cada vez más numeroso que siendo

y esas ayudas de emergencia social tienen que servir también para llegar a ayudar a esas familias que lo pasan mal y que no llegan a final de mes por lo tanto desde mi grupo lo que le seguimos pidiendo a su gobierno es que priorice en el gasto a la altura del año en el que estamos seguramente

de cuestiones que no son tan esenciales que pueden ser aparcadas para otro momento pueden ser de alguna manera vinculadas a las partidas presupuestarias de gasto social como estas en concreto o como las mencionadas anteriormente de las ayudas a la conciliación familiar

que su gobierno ha cumplido con una multa impuesta y con un acuerdo interinstitucional y han sido ustedes capaces de encontrar veintiuno millónes de euros para satisfacer esa obligación

y también quiero recordarle que en breve cuando tengamos la ley municipal en vigor el proyecto de ley municipal admite el criterio de los ayuntamientos de crear un programa plurianual de necesidades y establecer unos recursos mínimos a cada municipio luego en la cabeza del gobierno a la hora de elaborar esta ley

esta idea porque vamos a tener que esperar en un año como este en el que la crisis afecta muy directamente a las familias y a las personas a tener la ley municipal aprobada y yo comparta y sabe usted que tenemos disposición desde mi grupo

y seguramente en el tema de las ayudas de emergencia social deberemos dar una vuelta porque el órgano pagador y el órgano distribuidor de las ayudas no es el mismo y habrá que establecer unos criterios razonables e igualitarios entre todos pero la apuesta estratégica debe ser adoptar medidas inmediatas para dar una respuesta a quienes nos reclaman hoy con urgencia

como remanente del gobierno a final de año utilicen el dinero para la gente que lo necesita eskerrik asko mendia andrea lehendakari jauna zurea da hitza

porque lo de la multa no va a costa de lo que pueda ser la recaudación de los sobrantes de los departamentos lo sabe usted perfectamente y no plantee usted lo de la deuda

y que nos obliga a todas las administraciones a cumplir con

yo quiero decir que lo importante está cubierto todas las personas que tienen una necesidad social

toda necesidad básica está cubierta por la renta de garantía de ingresos la ayuda complementaria debe ajustarse a la capacidad presupuestaria y usted ha hecho la referencia también órgano pagador órgano distribuidor en cualquier caso el compromiso adicional con las ayudas de emergencia social

quién es el gobierno cuál es el gobierno que ha incrementado en sus presupuestos en los dos últimos años siendo que el año dos mil doce se mantuvo el mismo presupuesto en la legislatura anterior

algunos se han ajustado a las mismas y otros las han incrementado con sus presupuestos con sus propios presupuestos

compartida en lo referido a las ayudas de emergencia social y así la debemos gestionar beraz nik uste dut gure gizarte sistema hobetzeko eta sustatzeko

akordioa berritzeari buruz barrio jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta señorías lehendakari miembros del gobierno

señora consejera hoy nos tiene que dar

tiene que dar información porque estamos en octubre de dos mil catorce y ya debemos de saber algo

entre las instituciones vascas y la fundación guggenheim en relación con el museo de bilbao con el museo guggenheim bilbao para diciembre debe estar firmado ese acuerdo de gestión de dos mil catorce y como todos sabemos se constituyó en julio de dos mil trece un grupo de trabajo se elaboró un documento base la primera quincena

de negociaciones por lo que sabemos ahora estamos en un punto de llegada

en el parlamento también trabajamos en dos mil doce en relación con este tema en la ponencia parlamentaria que usted conoce con sus

de enfoque y de ayuda a esa negociación pero hoy tenemos que saber algo de cómo está esa negociación porque el patronato se reunió el pasado veinte de junio

con su asistencia y otros miembros del patronato el representante de las empresas y según lo que sabemos

fueron informados de los contactos de las administraciones vascas y la salomón

sea exitoso el acuerdo de gestión del museo guggenheim bilbao entonces nosotros queremos saber y queremos saber datos ya de verdad es decir

cómo valora la situación de las negociaciones del acuerdo de gestión del museo guggenheim bilbao entre las administraciones

como sabe llevamos tiempo trabajando en ello y lo estamos haciendo partiendo de tres premisas básicas

que se traduce en una única voz en defensa de nuestros intereses máxima discreción necesaria e imprescindible para que un proceso tan importante como este

y respeto y consideración a las recomendaciones del dictamen de la ponencia aprobado en esta sede parlamentaria barrio jauna hauek dira beraz lan ildo nagusiak

absolutamente insuficiente absolutamente insuficiente estamos a poco más de dos a meses de tener que firmar ese acuerdo ese acuerdo

y su desarrollo ha sido el que ha sido y nosotros desde luego que reconocemos el efecto

intervenciones parlamentarias pero tenemos que darnos que darnos cuenta de que el efecto exitoso del guggenheim bilbao lo puede ser todavía mucho más

de la negociación esas son las claves de la negociación y sobre todo el que sea más potente la parte vasca la fuerza cultural la fuerza dentro de esa

efectivamente la colaboración entre las instituciones era básico el que las instituciones vascas tuviesen que colaborar en mayor medida que anteriormente

discreción desde luego pero discreción no es falta de información y sobre todo discreción no es que nos enteremos por algún medio de comunicación de cómo están los avances y de cómo están las cuestiones

eso no es discreción así que nosotros queremos información quedan dos meses y respecto a la ponencia por supuesto ustedes ya se han comprometido a respetar las recomendaciones de la ponencia las recomendaciones de la ponencia que son muy importantes que son de referencia

de la ponencia donde ponen el acento es precisamente en fortalecer después de la experiencia que hemos visto que hemos comprobado

todavía tiene debilidades tiene insuficiencias puede ser mucho más potente dentro de esa generación tractora de cultura que es el museo guggenheim bilbao y que eso
usted todavía nos tiene que dar información y la tenemos pendiente muchas gracias eskerrik asko barrio jauna uriarte andrea zurea da hitza

edificaremos nuestras decisiones desde el consenso de las instituciones vascas con una única voz de forma que nuestros intereses queden

y esperamos que muy pronto la propuesta definitiva sea planteada al patronato para su aprobación

a responder el tema es que el día veintitrés de julio de este mismo año el gobierno vasco y las diputaciones forales pactaron en el consejo vasco de finanzas

pero lo cierto es que no hubo el más mínimo atisbo de autocrítica por parte de las instituciones representadas en dicho órgano es decir nadie explicó a los ciudadanos quiénes son los responsables

de las instituciones vascas es decir el conjunto de los ciudadanos vascos tengamos que pagar nada más y nada menos que treinta millónes de euros por esa multa impuesta por la unión europea nadie asumió ningún tipo de responsabilidad nadie pidió

nadie ha explicado nada a los ciudadanos nadie ha admitido que se haya equivocado más allá de entretenerse en fomentar luchas territoriales para desviar la atención de lo verdaderamente importante y lo importante es que los ciudadanos van a tener que pagar esos treinta millónes de euros lo cierto es que

en todo este tiempo ni durante ni tras la reunión del consejo vasco de finanzas la más mínimo autocrítica esto es importante la impone el tribunal porque las diputaciones forales hicieron caso omiso a las exigencias europeas para que las ayudas entregadas a las empresas fueran recuperadas en el plazo establecido por esto se impone la multa los responsables de las tres diputaciones forales mirar para otro lado desatender las exigencias legales de la unión europea rechazar reiteradamente los sucesivos requerimientos actuar de un modo

y pretender esquivar la ejecución de la sentencia provocando como digo unas pérdidas de treinta millónes de euros que tenemos que pagar el conjunto

quiénes son los responsables de este lío absolutamente monumental deben depurarse responsabilidades políticas nosotros pensamos que sí que deben depurarse

y en nuestra opinión los responsables evidentemente son una serie de representantes institucionales que podemos definirlos como

e incluso mentirosos cuya actitud nos ha llevado a tener que pagar a escote el conjunto de los ciudadanos vascos nada más y nada menos que treinta millónes de euros

por la unión europea sí o no van a ser los ciudadanos los que en última instancia van a tener que pagar esa cantidad de dinero sí o no señor consejero quiénes son los responsables

treinta millónes de euros quiénes son según usted los responsables políticos y según usted deben depurarse o no responsabilidades políticas nosotros pensamos lo cierto es que la fiscalía superior de la comunidad ya ha abierto diligencias veremos en qué acaba todo esto pero en todo caso en nuestra opinión responsables políticos

nacionalista vasco el partido nacionalista vasco es el culpable y el responsable de que los ciudadanos tengamos que pagar treinta millónes de euros y en concreto los que gobernaban

los señores del partido popular pero fundamentalmente es el partido nacionalista vasco porque la multa se impone como consecuencia de la actitud de las diputaciones forales que se negaron reiteradamente a recuperar las ayudas empresariales estas son las verdades de los hechos y yo le pregunto por su opinión según usted
hay responsables o no amaitu da denbora

señor lehendakari no es mi intención en el desarrollo de esta interpelación

debatir sobre lo que ya está debatido en el seno de la comisión de investigación de epsilon y de hiriko ese debate ya se ha producido los grupos ya presentaron en su momento las diferentes propuestas sus alegaciones

zuzenketak presentaron todo lo que consideraban que había que incluir en ese dictamen finalmente aprobado en ese dictamen se apuntan responsabilidades políticas y se realizan recomendaciones al gobierno vasco y a otras instituciones sobre qué es lo que debe hacerse en el futuro para que hechos semejantes a ocurrir lo cierto es que el dictamen se aprobó el pasado día diez de julio en la comisión correspondiente y es por esto que nosotros realizamos esta interpelación para conocer qué es lo que iba a hacer a partir de la aprobación de ese dictamen qué decisiones iba a tomar el gobierno a partir de la aprobación de ese dictamen y lo cierto es que ayer mismo en el pleno de este parlamento se aprobó el dictamen y es muy claro y dice lo que dice y ha sido aprobado por una amplísima mayoría parlamentaria todos los grupos han apoyado este dictamen salvo

nacionalista vasco esta es la realidad por lo tanto hay un apoyo masivo extraordinariamente importante en relación a todo lo que se dice en ese dictamen

se relatan los hechos ocurridos y se apuntan una serie de conclusiones una serie de responsabilidades y una serie de recomendaciones que deberá tener en cuenta este gobierno se crea por lo tanto una comisión de investigación en su momento iniciativa planteada

con esos objetivos detectar las responsabilidades políticas en este fiasco monumental y en esta pérdida de dinero público

evidentemente hacer también las correspondientes recomendaciones a las diferentes instituciones para que esto no vuelva a suceder el dictamen

lo conoce y señala una serie de responsabilidades ya digo que cuando se crea una comisión de investigación uno de los objetivos fundamentales es ese señalar quiénes son los responsables políticos de una determinada actuación

estos responsables políticos están ya señalados en este dictamen se dice lo siguiente en relación a epsilon

en quienes han formado parte de los siguientes órganos por un lado las personas que formaban parte del consejo vasco de promoción económica que en su sesión número

declararon a lo presentado por epsilon como proyecto estratégico y propusieron al consejo de gobierno la concesión de una subvención de fondos estratégicos y por otro lado las personas que formaban parte del consejo de administración de la sociedad parque tecnológico de álava

y en relación con las operaciones de cesión de rango hipotecario y de compromiso de participación en ejecuciones hipotecarias manifestaron su conformidad con las referidas operaciones

y presidente de la red de parques tecnológicos de euskadi

se señalaran claramente los nombres y los apellidos de esas que formaban parte de esos consejos el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi votaron en contra y por eso los nombres y los apellidos concretos de estas personas no aparecen ahí pero sabemos quiénes son perfectamente

altos cargos del gobierno actual en concreto

del gobierno y hay otra persona que es viceconsejera del gobierno le preguntamos sobre las decisiones que el gobierno vasco va a tomar en relación

a las personas que una mayoría parlamentaria considera como responsables políticos de este fiasco monumental y de esta pérdida de más de sesenta

qué decisión va a tomar el gobierno va a hacer caso a lo que dice este dictamen o se va a negar a tomar las decisiones apropiadas y estas decisiones apropiadas me imagino que usted comprenderá

cuáles son o cuáles defiende upyd ya digo que cuando se crea una comisión de investigación es para algo el dictamen ha sido aprobado por lo tanto el gobierno en nuestra opinión debe tomar decisiones qué decisiones va a tomar el gobierno en relación a estas personas señaladas en ese

a pedirles su cese va a mantenerlas en sus cargos va a obviar lo que dice el dictamen va a obviar que estas personas son responsables de esa pérdida tan millónaria de dinero público en relación en concreto va a dejar que todo siga como está o va a considerar que personas que tuvieron esas responsabilidades y esa culpa puedan mantenerse en sus cargos va

su cese va a pedirles su cese señor lehendakari gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

señor maneiro quiero comenzar reconociendo las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre los casos de epsilon e hiriko aunque con la misma claridad afirmo que no las comparto en absoluto

el informe político elaborado y aprobado por los grupos parlamentarios de la oposición política a este gobierno ha concluido con la sentencia política deseada y predeterminada aunque tampoco fuera de su satisfacción plena según ayer pretendió y hoy pretende los proyectos empresariales de epsilon e hiriko nacieron hace más de cinco años usted dice que no es su intención debatir sobre lo ya debatido

como lehendakari en relación a esta cuestión durante cinco años dos gobiernos vascos las tres diputaciones forales y diferente ministerios del gobierno español

ha quedado probado que todos los informes técnicos y profesionales avalaron las decisiones adoptadas en su día esto

ayer se aprobó el dictamen y hoy nos encontramos en el parlamento vasco con su interpelación usted trató por todos los medios que el dictamen de la comisión de investigación incluyera responsabilidades individuales con nombres y apellidos la cámara no lo ha aprobado así pero usted a pesar de todo

a seis personas muy concretas por qué estas seis personas qué es lo que les distingue por qué ha seleccionado a estas seis entre las decenas

son seis personas cuyo único punto en común es que forman parte del actual gobierno su única pretensión señor maneiro es cargar toda la responsabilidad pública y política sobre estas personas concretas de este gobierno vasco sí

me pregunta usted qué medidas voy a adoptar contra estas seis personas y mi respuesta es que no encuentro en el dictamen ni en la auditoria del tribunal vasco de cuentas públicas

contra estas personas usted señor maneiro podrá seguir realizando su oposición política sin ecuanimidad proporción ni equilibrio pero lo que no va a lograr es que yo adopte decisiones contra personas

usted ha venido hoy con el único objetivo de repetir los mismos argumentos que toda esta cámara escuchó ayer de su boca

pero dado que usted parece que no escucha los argumentos de los demás yo hoy se los voy a repetir a pesar de que usted no haya entrado en el desarrollo de toda su intervención de ayer salvo

que es la acusación contra personas con nombres y apellidos concretos comienzo por reconocer una evidencia que nunca se ha ocultado

han sido dos proyectos de investigación que han resultado fallidos no han funcionado conforme a lo que se esperaba en los años dos mil ocho dos mil nueve dos mil diez

en aquel momento las decisiones esto ocurre todos los años en todos los gobiernos del mundo nadie tiene el don de la infalibilidad

hemos sabido que estos dos proyectos han sido fallidos y las causas han sido

hemos reconocido que se han podido cometer errores de valoración de los proyectos hemos reconocido que se pueden y se deben mejorar los procedimientos de evaluación

las normativas reguladoras de estas ayudas no nos cerramos en banda nuestra responsabilidad es aprender de los errores pasados para mejorar las decisiones futuras y es un compromiso que asumimos plenamente pero una cosa es el reconocimiento de un proyecto fallido y otra distinta hablar de corrupción y de levantamiento de bienes como ayer se hizo

media un abismo un abismo de medias verdades y falsedades que no voy a transitar en ningún caso insisto en que me refiero para fijar mi posición como lehendakari ante esta cuestión que ya se debatió ayer por mucho que usted

y usted habló de corrupción cuando está demostrado que ninguna de las personas citadas se ha beneficiado de un solo euro está demostrado que ninguna de las personas que formaban parte del consejo vasco de promoción económica que declararon a epsilon como proyecto estratégico se ha beneficiado

de la sociedad parque tecnológico de álava que usted hoy también ha mencionado se ha beneficiado no hay ninguna prueba ni siquiera indicio de corrupción en los órganos a los que se alude en el informe de la comisión y menos aún en las personas que usted refiere en su interpelación

que participó en las decisiones ninguno se ha llevado un euro de dinero público como lehendakari señor maneiro no voy a condenar a personas inocentes sin ser juzgadas sobre la base de un dictamen político parcial e interesado y plagado de medias verdades

usted sabe que las ayudas que se dieron a epsilon fueron en concurrencia competitiva con otros proyectos

con total transparencia esta es una verdad completa

usted sabe que ambos proyectos recibieron ayudas de diferentes instituciones no solo de dos gobiernos vascos distintos sino también del gobierno español y de las tres diputaciones forales

completa usted ha escuchado las declaraciones del secretario de estado que ha manifestado que el proyecto de investigación y desarrollo tecnológico presentado por epsilon era un proyecto viable e interesante y que por tanto merecía el apoyo de las administraciones públicas usted sabe

que el propio informe del tribunal vasco de cuentas públicas presentado en junio ha ratificado la legalidad de las actuaciones desarrolladas y esta también es una verdad completa

una comparecencia reprobada por el pleno del tribunal con esta contundencia que cito

al argumentar sustancialmente con opiniones particulares no amparadas por ningún acuerdo plenario no se ha ajustado a la función de representación

en cualquier caso señor maneiro subrayo lo importante el tribunal vasco de cuentas públicas ha dictaminado la legalidad de las ayudas usted sabe todo esto y a pesar de todo insiste en las supuestas responsabilidades políticas personales no pide usted responsabilidades políticas a todos los responsables no ni a todas las personas que participaron en la toma de decisiones no ni pide responsabilidades políticas por todos los proyectos de investigación

siguiendo su argumentación sería preciso exigir responsabilidades políticas a los responsables políticos o representantes políticos e institucionales que apoyaron

en presencia del propio presidente de la comisión europea sería preciso exigir responsabilidades

que en el gobierno vasco en la pasada legislatura subvencionaron y premiaron este proyecto político o siguiendo su argumento sería necesario pedir responsabilidades políticas

y a los responsables públicos e institucionales que deciden todos los días ayudas y subvenciones a proyectos de investigación o de nuevas empresas que acaban en fracaso no a usted solo y exclusivamente le interesa el escarnio público de seis personas seis personas que cuentan con el aval de legalidad en todas sus actuaciones y no es justo ni es ajustado

señor lehendakari ya le decía yo al principio que no he venido aquí a discutir de lo que ya se discutió

y de lo que ya se votó sabe usted lo que este parlamento dictaminó o no sabe usted lo que este parlamento dictaminó lo asume o no lo asume

ayer y efectivamente ahí están las personas aunque no estén citados sus nombres que formaban parte de esos consejos perfectamente claro está

hacia otras situaciones sea demócrata asuma lo que dice este parlamento una mayoría de esta cámara ha aprobado

que este dictamen se quedaba corto y que había más responsables y que el gobierno de españa también era responsable en la parte que le tocaba y seguramente habrá

los que están ahí efectivamente son claros y conocidos quienes son más allá de que efectivamente los nombres y los apellidos no se hayan incorporado dice que un servidor intentó

y se votó se votaron esas alegaciones y el resto de grupos o algunos grupos las echaron para atrás lo respetamos pero el dictamen y por lo tanto yo le pregunto por el futuro inmediato de determinadas personas que han sido citadas como responsables del fiasco epsilon y que forman parte de su gobierno porque es su responsabilidad

seguro que sí yo le pregunto por aquellas personas responsables que forman parte de su gobierno es evidente que ha habido mala gestión se dice en el dictamen que ha habido mala gestión y se dice quienes son los responsables van a seguir formando parte del gobierno esas personas que este parlamento mayoritariamente ha considerado como responsables de esa mala gestión

nosotros pensamos que tiene usted que cesarlas esa es nuestra petición no es ningún escarnio personal es lo que dice el dictamen no es lo que dice upyd el dictamen las señala como responsables no las señala como responsables no asume usted ni siquiera que el dictamen señala a esas personas que formaban parte de esos consejos

los grupos que votaron en contra de que aparecieran los nombres y los apellidos dijeron

quienes son salvo el partido nacionalista vasco evidentemente los demás grupos de la cámara hemos aprobado ese dictamen el dictamen es claro

su cese en nuestra opinión no puede mantener en sus cargos a personas que han sido consideradas por este parlamento como responsables del fiasco epsilon ya digo el dictamen no es de upyd el dictamen es del parlamento fue aprobado ayer asuma por lo tanto la democracia y asuma lo que dice este parlamento nosotros le pedimos el cese de todas estas personas efectivamente arantza tapia

juan miguel bilbao hernando lacalle rodrigo garcía

cárcamo forman parte de este gobierno especialmente dos personas destacadas como son arantza tapia

han sido consideradas por este parlamento como responsables del fiasco

no se rían porque tal como se está demostrando en los últimos tiempos bastantes problemas nos está el partido nacionalista vasco a la ciudadanía vasca los millónes perdidos en los fiascos epsilon e hiriko o los treinta millónes de euros de multa impuesta por la unión europea esa es la buena gestión del partido nacionalista vasco esa es la buena gestión de la que presume el partido nacionalista vasco millones

como consecuencia de una serie de actuaciones absolutamente irresponsables eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

en la apelación que usted hacía a que yo sea demócrata para ratificarme y todos los días tengo que hacer ese propósito de no caer

señor maneiro sé tan bien como usted que este parlamento aprobó ayer el dictamen de conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria y digo que lo sé tan bien como usted ahora usted lo asume

sí yo lo respeto desde luego pero no lo comparto y he vuelto a reiterar el porqué he reconocido que estos dos proyectos

como otros muchos que se aprueban cada mes en madrid en bruselas o en euskadi ocurre permanentemente pero no puedo admitir

pero ayer sí y lleva toda una temporada hablando de corrupción y de corruptelas a la ligera señor maneiro no lo puedo admitir y no puedo admitir que califique como corruptelas o como corruptas a las personas técnicas y responsables

que apoyaron estos proyectos obrando de buena fe y en estricto cumplimiento de la normativa vigente sí señor maneiro menee usted la cabeza todo cuanto quiera pero sí

actuaron dentro de la legalidad y que no obtuvieron ningún tipo de beneficio manifiesto mi compromiso personal y el de mi gobierno con la transparencia

y a dar la cara cuantas veces sea necesario pero no me pida juzgar anticipadamente y mucho menos tomar decisiones con respecto a personas

son inocentes y por supuesto los miembros que forman parte de este gobierno todos ellos esta no es una afirmación gratuita

que ha dictaminado la legalidad de las ayudas concedidas no exija al lehendakari que asuma decisiones cuando ni el tribunal vasco de cuentas públicas ni los jueces se han pronunciado por muchos gestos que haga señor maneiro no me va a interrumpir señor maneiro a usted

la verdad completa a usted solo le interesa utilizar este caso en contra del actual gobierno y del partido nacionalista vasco este es su único

es con la ética con la política con la transparencia con la justicia con el respeto a la dignidad y la integridad de las personas y mi compromiso es con la verdad

espainiako aurrekontuen ehuneko berrogeia el sistema de protección en euskadi podemos decir que es uno de los más avanzados de toda españa no solo de toda españa sino de como decía del resto de españa sino también de europa

más solidarios con personas en situación de necesidad y con un desembolso económico muy superior al que realizan otras comunidades autónomas precisamente con el esfuerzo de todos los ciudadanos

públicas y en concreto el gobierno vasco en la financiación de las prestaciones económicas previstas en la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social

el departamento de empleo y asuntos sociales destina más de cuatrocientos millónes a sufragar estas ayudas

en concreto cuatrocientos treinta y cinco millónes de euros y esta cantidad representa el cuarenta por ciento

en rentas destinadas a personas en situación de necesidad de toda españa y según los datos facilitados por el gobierno vasco en respuesta parlamentaria a este grupo se ha detectado la cantidad de cincuenta y nueve

en prestaciones económicas gestionadas por lanbide servicio vasco de empleo durante los años dos mil doce dos mil trece es decir los dos primeros años de gestión por parte de lanbide de estas prestaciones económicas y de dicha cantidad también según los datos desvelados en dicha respuesta parlamentaria

cincuenta y seis coma tres millónes de euros sí me gustaría hacer inicialmente

en ineficiencias de la administración y no hablamos de fraude tal y como

pregunta al salir a la luz pública creo que sería más correcto en vez de hablar cobros indebidos

si estamos hablando como usted decía de ineficiencias o irregularidades en lanbide como

este gobierno va a tener oportunidad de detallar a qué se refería exactamente

porque para que haya un cobro indebido obviamente tiene que haber primero un pago indebido hemos conocido recientemente que lanbide servicio vasco de empleo ha remitido a las diez mil misivas a perceptores de rgi que parece ser que recibieron más dinero del que tenían que recibir en concepto de estas prestaciones una campaña que parece ser que tiene contenido informativo

ustedes señores del ejecutivo se han visto forzados por la opinión pública a poner en marcha una campaña

mucho nos tememos que esta campaña vaya a tener resultados y además va a generar una frustración clara

esta cantidad hemos formulado una pregunta para que nos conteste

entre otras cuestiones como no podía ser de otra forma el coste total de la campaña y los medios empleados no vaya a ser que se gasten más en las cintas

este nuevo dato pone de manifiesto que una vez más el sistema no funciona y el fracaso de la gestión en lanbide agerian berriro geratu da

kudeaketaren porrota se aprobó un plan de trabajo en mayo de dos mil trece en el que se priorizaban los asuntos a tratar y se nos decía

que la primera prioridad era asegurar el acceso a prestaciones y el cumplimiento de los plazos legales de resolución se habrán agilizado plazos de resolución efectivamente era una cuestión pendiente pero

que muchos no se han resuelto de forma adecuada o de forma absolutamente inadecuada y me estoy refiriendo al resultado de cincuenta y seis millónes de euros sin recuperar

según también las explicaciones que se nos dieron en ese momento esa priorización provocaba que la revisión periódica de los expedientes se demorara igual que los procedimientos de reclamación de

expedientes también en este parlamento para articular un procedimiento

el señor consejero y el director de lanbide una actitud responsable va a hacer que pongamos en marcha todos los procedimientos necesarios para recuperar dichos cobros indebidos queremos saber cuál es el resultado de ese plan piloto

entre esos procedimientos si estaba ya prevista la campaña de enviar las cartas concretamente nos decía el señor consejero nosotros el plan que tendríamos

de posibles cobros indebidos si son achacables a la administración

por lo tanto estableceríamos un plazo de un año y pico para concluir con todas y cada una de estas resoluciones

cómo está esta cuestión señor consejero o señor lehendakari que es a quien va dirigida la interpelación

de las personas que están dentro del sistema de protección afirmación que se refleja también en el porcentaje que se ha dado en una respuesta parlamentaria que es de un dos por ciento de las cifras de otras comunidades autónomas o de las que ofrecía el propio inem lanbidek bestalde ez du betetzen lan merkatuen bitartekaritza

el señor consejero en su comparecencia al explicar las líneas maestras en su departamento decía que lanbide tiene dificultades para cumplir su cometido principal que es ejercer la intermediación laboral que lanbide no hace en estos momento intermediación laboral que es la principal razón de su existir qué han hecho y qué están haciendo en este ámbito concreto

no estamos gestionando bien también en el plan estratégico de lanbide presentado en esta cámara

se hablaba de reorientar el modelo de gestión de lanbide hacia un sistema de empleo eficaz y seguía diciendo que había que reforzar el objetivo de la intermediación en el mercado de trabajo por no hablar de la rpt todavía pendiente donde se van incumpliendo todas las fechas dadas mejor que no den ninguna más

ha señalado por activa y pasiva que la relación de puestos de trabajo de lanbide era fundamental por cierto sin esa rpt dicho

y se incorporaron aportaciones de los grupos quedará claramente en papel mojado recientemente el señor consejero de empleo y asuntos sociales ha señalado entre otras cuestiones

cincuenta y nueve millónes de euros o cincuenta y seis que todavía están sin recuperar yo creo que va a tener oportunidad de responderme aquí por lo tanto no hace falta

ya existen múltiples controles o no es el momento de modificar la normativa vigente no es el momento de abrir nuevos debates todas estas cuestiones nos la decía

meses por eso queremos saber señor lehendakari porque va dirigida la interpelación a usted

si es propósito del gobierno vasco mantener intacto el actual sistema de prestaciones

un nivel de irregularidades que supera los cincuenta y nueve millónes de euros señor lehendakari hoy este gobierno tiene la oportunidad de retratarse y desvelar las actuaciones que va a poner en marcha para dar la vuelta a esta situación para dar la vuelta a la desastrosa y nefasta gestión en lanbide

estamos en el ecuador de la legislatura y no vale seguir dando la espalda a la realidad

o seguir mirando para otro lado entre otras cosas porque para eso tienen ustedes la responsabilidad de gobernar

hay que atajarlos porque sino corren el riesgo de enquistarse y acaban convirtiéndose en verdaderos problemas con consecuencias muy negativas para la ciudadanía besterik

eta zuk ondo irakurri duzu es propósito del gobierno vasco mantener intacto el actual sistema de prestaciones sociales por considerar poco preocupante un nivel de regularidades que supera los cincuenta y nueve millónes de euros en el país vasco horri erantzutera

erakunde guztien artean lankidetzan aritzearen printzipioa señora garrido el sistema de prestaciones sociales se implantó sí en euskadi hace más de veinticinco años y durante estos años se han mantenido intacto los principios de solidaridad de consenso de colaboración

pues me voy a remitir a los hechos objetivos lo que ha ocurrido también es que altos responsables institucionales del partido popular han denunciado fraudes en las ayudas sociales lo han hecho a través de los medios de comunicación pero hasta la fecha no han aportado ninguna prueba o dato concreto que contribuya a poder atajar ese fraude

que altos responsables políticos parlamentarios e institucionales del partido popular han cuestionado el marco normativo legal que soporta las prestaciones sociales en euskadi

no han presentado ninguna iniciativa para mejorar esta normativa legal esto es lo que ha ocurrido y esto es lo que ha cambiado desde hace veinticinco años

sobre todo porque percibo detrás de esta actitud una clara intención de cuestionamiento general del sistema vasco de protección social y me preocupa profundamente que la denuncia

realizada a través de los medios de comunicación no venga apoyada por una documentación concreta que permita corregir estos hechos me preocupa que se haya focalizado este tema en una serie de colectivos específicos y digo bien

de inmigrantes del conjunto del colectivo de inmigrantes en unos colectivos específicos me preocupa que se ha llegado a pedir la supresión de ciertas ayudas sociales para ciertos colectivos

del gobierno vasco para reconducir esta cuestión desde los cauces institucionales de gestión y control que compartimos que sí lo hemos hecho

también le reconozco que estas preocupaciones no reduce un ápice en nuestras ocupaciones

somos conscientes no sé si me está escuchando más control de las ayudas sociales es más justicia social durante estos veinticinco años el sistema de protección social no ha permanecido intacto se ha adaptado se ha corregido se ha mejorado

que durante estos veinticinco años la gestión de la renta de garantía de ingresos ha correspondido primero a las diputaciones forales y que fue en la anterior legislatura la que ustedes apoyaban al gobierno que tenía la responsabilidad de gobierno en la anterior legislatura cuando se optó la decisión de transmitirla a lanbide

se ocupa de la gestión y del control de las situaciones de fraude y lo hace en colaboración con todas las instituciones públicas lanbide señora garrido cruza los datos de los perceptores de renta de garantía de ingresos y de la prestación complementaria de vivienda con la tesorería de la seguridad social

esas cifras como bien ha indicado usted se corresponden con los ejercicios dos mil doce y dos mil trece legislatura anterior y legislatura presente

y al gobierno anterior y le diré en todo caso que los cobros indebidos tal y como usted planteaba también una consideración no suponen necesariamente fraude falta de control o error en la gestión los cobros indebidos se generan normalmente por desconocimiento o por descuido de las personas perceptoras o por la propia dinámica de la tramitación administrativa insisto en que esta realidad la hemos dado a conocer con transparencia y se encuentra controlada

pero no cabe duda de que la estamos afrontando con determinación me pregunta usted si el propósito del gobierno es mantener intacto el sistema de prestaciones sociales

mejorando el sistema durante veinticinco años nunca se ha mantenido intacto tampoco ahora debemos hacerlo y a este parlamento le corresponde debatir y acordar los cambios normativos que considere oportuno este parlamento es también usted señora garrido es también el parlamentario señor maroto es también el grupo del partido popular

tal y como se ha hecho hasta la fecha y la última vez creo que haciendo referencia a este tema

fecha reciente aun cuando sea ya de hace seis años el veintitrés de diciembre de dos mil ocho lo recordará porque usted misma y todo su grupo aprobó esta ley

mientras no se apruebe una nueva para esto señora garrido ustedes podrían proponer también su modificación algo que no han hecho durante todos estos años

muy ocupados en el cuestionamiento público olvidando también la responsabilidad parlamentaria en cualquier caso insisto en lo que he dicho en toda la intervención no estamos dispuestos a mantener intacto el sistema nunca ha sido así y nunca deberá serlo

se aprobó el día veintitrés de junio en la comisión interdepartamental de publicidad veintitrés de junio y fue un compromiso ante este parlamento ante este parlamento la campaña del partido popular cuestionando las ayudas a colectivos de inmigrantes se inició el día quince de julio aprobada quizás por la comisión electoral del partido popular

no me consta que tengamos esa comisión a la que está haciendo referencia imagino que el partido nacionalista

aburto pensaba que iba a salir él porque tenía muchas cosas que decirme pero en cualquier caso me alegro que haya salido usted porque era

la pregunta efectivamente ingente cantidad de recursos públicos que se destinan cuatrocientos treinta y cinco millónes de euros presupuestados este año que no sabemos si serán

del gasto de toda españa y eso lo que conlleva es que el sistema tiene que ser verdaderamente justo

este gobierno cuando habla del dato es que el dato

no han recuperado todavía cincuenta y seis millónes de euros y por eso le preguntamos concretamente como el señor consejero decía que tenía que mantenerse el sistema intacto y que rechazaba cualquier modificación que si a tenor de esa cifra que desde luego a nosotros nos parece preocupante

les parece también muy preocupante pues si ustedes pensaban hacer algo porque es que mire si serían más diligentes en recuperar parte de ese

dado ese dinero y sobre todo en algunos casos concretos a ineficiencias de la propia administración pues quizás tuviéramos más dinero por ejemplo para llegar a financiar todas las solicitudes de las ayudas a la conciliación entonces yo creo que no estamos no se puede frivolizar con este tipo de cosas porque al final

pues se dejan de hacer cosas que son muy importantes y que se podrían hacer si ese dinero se empleará obviamente correctamente y como vemos señor lehendakari que ustedes no van a hacer nada no se preocupen que lo haremos nosotros tenemos el compromiso de traer aquí modificaciones y las traeremos

duda y modificaciones para mejorar el sistema oportunidad de vincular a la empleabilidad claro

con la transferencias de las políticas activas de empleo que por cierto ustedes ya se encargaron de retrasar con el señor zapatero pero que entonces usted era el presidente del ebb en esas negociaciones

es que era una oportunidad para conectar estas prestaciones económicas a la empleabilidad para que de una vez por todas desde luego nosotros creemos en ello las personas que están en el sistema

tengan una oportunidad porque esa es la verdadera integración de todas las personas el darles una oportunidad para que salgan del sistema de protección

para que eso sea posible tiene que ser incentivador y no desincentivador y ese sistema para que cumpla sus objetivos y lanbide cumpla sus objetivos de empleabilidad que es u principal objetivo según nos decía hace pocos meses el consejero en esta cámara tendrá que incrementar esas cifras de intermediación que actualmente están en un dos por ciento muy por detrás de comunidades autónomas como extremadura que no suele ser un espejo en el que ustedes se miran

por lo tanto ustedes como balance de gestión en lanbide del que es titular el departamento el señor aburto tienen un balance de gestión muy malo nueva campaña que han puesto en marcha para recuperar esas cantidades se constata nuevamente un fracaso en la gestión porque no son capaces ni articular un procedimiento y eso que decían que iban a hacer todo lo posible para recuperar esas cantidades de paso también

que ahora les piden dinero que muchas de ellas obviamente no lo tendrán por lo tanto fracaso claro en la gestión en lanbide por parte de su consejero y por parte

si no tenemos una rpt y nos presentan hace tres meses un plan estratégico para lanbide base y cuya clave para su puesta en funcionamiento es tener una rpt y no tenemos la rpt elaborada se nos decía en diciembre se nos decía en junio ustedes qué están haciendo en lanbide

es un desastre no está ni cumpliendo sus objetivos ni sus objetivos ya ustedes

que pagan de más y luego no articulan los procedimientos correspondientes para devolver esas cantidades por lo tanto yo creo que sería conveniente y mire señor urkullu el señor maroto lo que ha puesto de manifiesto es una realidad que me imagino que sus señores alcaldes

también tratarán de hacer porque poniendo encima de la mesa realidades a los ciudadanos es como se está de cerca de los ciudadanos
que es lo que tiene que hacer cualquier dirigente político y cualquier dirigente con responsabilidades eskerrik asko garrido andrea denbora amaitu zaizu

que yo presidía en aquel momento hizo todo lo posible por retrasar las políticas activas de empleo como transferencia a este gobierno

las políticas activas de empleo y escenificó la posible transferencia de las políticas activas de empleo y era un gobierno que estaba apoyado por ustedes tenía mayoría absoluta por lo tanto y que no era cuestión que el partido nacionalista vasco pudiera poner cortapisas

nuevamente cuando ustedes apoyaban al gobierno español o al gobierno del partido socialista del gobierno vasco y se escenificó aquella

zanjar esta cuestión insiste usted en una interpelación en la que me mezcla

con lo que luego es la preocupación por la rpt en lanbide por el funcionamiento de lanbide que no tiene nada que ver o poco con lo que es el mantenimiento del sistema

ustedes una iniciativa es lo que yo he planteado en el debate de política general la voluntad de un consenso sobre lo que son las políticas sociales el conjunto de las políticas sociales

guztioi yo le garantizo señora garrido que el gobierno vasco que asume desde el año dos mil trece diecisiete de diciembre del dos mil doce

vamos a seguir trabajando por aumentar el control y por reducir los abusos si los hubiere le garantizo que lo vamos a hacer en un marco de colaboración con todas las instituciones

y los ayuntamientos seguiremos cruzando datos e información para la mejora de la gestión cuanta más información y más concreta tengamos mejor podremos actuar no comparto ni el fondo ni la forma de las invectivas lanzadas por el partido popular en esta cámara y reitero mejorar el control y luchar contra el fraude sí reducir el estado de bienestar y la cobertura social en euskadi no controlar las ayudas

suprimir las ayudas no reitero todos somos iguales ante la percepción de ayudas sociales no hay beneficios especiales a colectivos específicos de inmigrantes mismos requisitos mismos criterios y la realidad es que hay mayor porcentaje

porque sufren más la exclusión y la pobreza estas personas son

son nosotros no son ellos y yo pido a la sociedad vasca que sea solidaria con la parte más débil de nuestra sociedad tal y como ha demostrado en estos últimos veinticinco años quiero que la sociedad vasca sea conocedora de que no es cierto que exista una situación de fraude generalizado

actuamos en coordinación con el control de las ayudas para eliminar los abusos lo vamos a seguir haciendo porque reitero que más control significa

la solidaridad son valores de este pueblo en su conjunto eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa laura garrido

es uno de los valores de este pueblo no entendemos que ustedes hayan recortado las ayudas a la conciliación ayudas a las familias vascas no entendemos esa decisión

no entiendo como usted señor lehendakari a la cabeza de este gobierno

de recortar las ayudas a uno de los colectivos que lo puede estar necesitando y de echo lo está necesitando en estos momentos de crisis económica la ley de

para que las parejas puedan tener los hijos e hijas que deseen

para que las familias a cargo con hijos puedan alcanzar la convergencia

y las políticas de conciliación son una herramienta para fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y afianzar las políticas de empleo en uno de los colectivos en los que es necesario incidir el decreto ciento setenta y siete barra dos mil diez

sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral contempla la regulación de las ayudas que en el marco de la política de conciliación de la vida familiar y laboral otorga el gobierno vasco a través del departamento de empleo de asuntos sociales

de actuación la ley cuatro barra dos mil trece de veinte de diciembre por la que se aprueban los presupuestos generales de la comunidad autónoma del país vasco de euskadi para el ejercicio dos mil catorce dispuso en el programa tres mil ciento veinticuatro de política familiar y comunitaria un importe por diecisiete millónes trescientos veintidós mil setecientos ochenta y seis

económicas para la conciliación de la vida familiar y laboral previstas en los apartados a b y d del artículo uno del citado decreto al que he hecho

en virtud de la resolución de veintidós de agosto de dos mil catorce

sociales del consejero de políticas sociales hace público el agotamiento del crédito presupuestario consignado para el ejercicio dos mil catorce para la concesión de las ayudas relativas

queremos denunciar el retroceso claro en política social que está llevando a cabo este gobierno vasco mientras se le llena la boca de no recortes gizarte

atzerapena salatu nahi dugu en los dos últimos años se han producido recortes en las ayudas a la conciliación primero con una reducción a la mitad de los presupuestos y a esto hay que añadir que las ayudas para este año se han agotado en cinco meses y solo se han cubierto las solicitudes formuladas

febrero no nos vale que nos diga el señor consejero esta mañana aquí que es que se van a pagar pero se van a pagar con retraso es que las familias lo que esperan es que se les pague las ayudas cuando les corresponden y cuando lo solicitan porque para eso lo solicitan

en un momento determinado y planificar y organizar su vida por lo tanto no nos vale señor consejero que nos venga este gobierno

se van a pagar con cargo al siguiente como nos pasaba con los planes de empleo también el retraso no era el dinero correspondiente de los planes de empleo esos veinte millónes de euros a los ayuntamientos

dónde están las prioridades de este gobierno desde luego en la política social y en la política familiar y en la política de conciliación vemos claramente que no porque ustedes por qué no complementan unas ayudas que claramente en el anexo de créditos ampliables en el punto catorce se señalan que son créditos ampliables es que en el punto catorce se dice los créditos destinados a satisfacer las ayudas económicas del apoyo a las familias

la conciliación de la vida familiar y laboral establecidas en la ley trece barra dos mil ocho

en la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social son derecho subjetivo

ampliables porque aparecen en este listado igual que deberían de serlo las ayudas a la conciliación porque es que aparecen aquí cómo ustedes plantean en los créditos ampliables en el punto catorce que las ayudas correspondientes y que tienen su base en la ley de apoyo a las familias sean ampliables y luego no las amplían yo espero que ese término sea aclarado hoy en esta

pero en cualquier caso constatamos que la política social no es una prioridad para este

a las ayudas a la conciliación con unas ayudas que son

afianzar las políticas de empleo en un colectivo en el que es necesario incidir

a uno de los sectores más vulnerables en el mercado de trabajo es que cuando tratamos aquí planes de empleo y hablamos de políticas de empleo hablamos del colectivo femenino como uno de los colectivos en los que hay que incidir y uno de los colectivos en los que está incidiendo especialmente la crisis económica y luego llegan ustedes

cierran el grifo a las ayudas a la conciliación y no las amplían cuando tienen una previsión de ampliación en los supuestos de créditos ampliables desde luego con este nuevo recorte este gobierno demuestra una falta de compromiso con las familias vascas puesto que su negativa a garantizar estas ayudas hasta este año y no nos vale que nos diga que se van a pagar el año que viene

tiene posibilidades de hacerlo porque estamos hablando de un crédito ampliable

y por cierto si se está hablando de que hay una mayor recaudación parece ser en un cinco por ciento por lo tanto

recaudación por qué recortan en la política social dónde va a ir ese dinero

se retrata y evidencia que su eslogan

puesto que cuando tiene la oportunidad de demostrar que es una prioridad en su agenda política no lo hace y cuando tiene posibilidades de hacerlo porque son créditos ampliables no lo hace

de complementar esas ayudas hasta llenar la financiación correspondiente hasta cubrir todas las solicitudes formuladas

y de este gobierno cuando nos decía que lo importante son laspersonas cuando se ha cerrado el grifo a las ayudas de la conciliación

que tiene claras repercusiones y consecuencias para las familias vascas en momentos de especiales dificultades por eso le preguntamos concretamente señor lehendakari

cuando encima como le he señalado son créditos ampliables esperemos obtener
una respuesta en relación a esta cuestión besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea erantzuteko

mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok lo primero que quisiera

como ya lo he hecho antes en euskera es que las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral

lo sabe usted bien señora garrido lo que ha ocurrido es que se ha agotado

que pudimos habilitar este año y que en consecuencia han cesado los pagos

o bien se apruebe el próximo presupuesto la partida es ampliable y usted sabe también por técnica presupuestaria

nada impide que se pueda ampliar usted lo sabe pero este gobierno ha dicho por activa y por pasiva que no va a gastar el dinero que no tiene y para ampliar una partida lo que hace falta es económicos que posibiliten esa ampliación el decreto que regula estas ayudas sigue en vigor

lo dijo el lehendakari en el debate de política general no oculto los problemas decía y no los ocultamos pero encima de la mesa como comprenderán esta ha sido una decisión muy difícil dolorosa

puede hacer gestos señora garrido yo no puedo hacerlos pero usted sí suponíamos que podía ocurrir

a estas alturas del año pudiéramos haber generado algunos remanentes del conjunto del departamento para ampliar esta dotación

por lo menos tanto como usted y también de la solidaridad intrafamiliar y también de la intergeneracional

lo decíamos antes es proveedora de cuidados es probablemente una de las principales proveedoras de cuidados para el ejercicio tanto de la parentalidad positiva como de la maternidad y para el cuidado de las personas que están en una situación de dependencia

no habría seguramente presupuestos públicos capaces de soportarlo por eso son necesarias políticas de conciliación y porque la administración nunca va a ser capaz de sustituir a la familia

complementaria de la misma recuerden también que el año pasado en los últimos meses conseguimos remanentes del departamento de ahorros del departamento utilizando terminología más correcta conseguimos dos millónes de euros que fueron destinados en aquella ocasión

de emergencia social creemos

de las ayudas a la conciliación pensamos incluso que no siendo un derecho subjetivo como no son seguramente sirven más

las ayudas a las familias por hijos e hijas a cargo un apoyo económico legislado con carácter de derecho subjetivo este último

y por eso cumplimos unas y las otras están pendientes de cuál sea la dotación presupuestaria por esta razón

nuestra prioridad es cumplir la ley y la prioridad a la hora de dotar los fondos la tienen las ayudas por hijos

creo necesaria una reflexión sobre si las ayudas deben ser en todos y cada uno de los casos por todos y cada uno de los hijos tengo dudas

en el caso del primer hijo realmente las familias demuestran por estudios existentes que realmente el gap se encuentra a la hora de tener el segundo hijo que es precisamente el que garantiza el relevo generacional

de reflexión motivado también por esta situación que estamos viviendo en este caso con la dificultad para el abono de las ayudas a la conciliación y estamos y creemos que debiéramos dejar

consensuada una estrategia vasca de apoyo a la natalidad

pero es más usted sabe también que hay otras ayudas que bien por ley o bien por su naturaleza tienen prioridad para el departamento de empleo y política sociales y para el gobierno

lo mismo ocurre con las ayudas a familias por hijos e hijas

a situaciones de necesidad comprendemos que muchas personas

o han pedido una excedencia con la previsión de recibir estas ayudas y que un mayor retraso en su pago supone un trastorno pero en el peor de los casos

que aumente el retraso actual en su cobro pero no tengan duda de que van a cobrar las ayudas no tienen una cuantía económica muy elevada oscilan entre los dos mil cuarenta y seis euros y los tres mil doscientos cincuenta y cinco sea cual sea la cantidad entendemos no obstante

por cierto usted mencionaba que tiene un efecto sobre la incorporación de la mujer al mercado laboral

no sé si realmente el efecto que tiene es sacar a la mujer del mercado laboral porque los datos nos dicen señora garrido

y es una preocupación la abrumadora presencia femenina

de conciliación más de un noventa por ciento de las ayudas son solicitadas por mujeres que salen del mercado laboral

que el agotamiento del crédito para las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral supone un retraso un doloroso retraso

pero no una desaparición de los mismos señora garrido una reflexión también para el partido popular

somos la única comunidad en el estado que mantiene este tipo de ayudas

pero la única comunidad en el estado como decía antes esta situación no es agradable para nadie y menos aún para este consejero y el argumento de ser los únicos en el estado que mantienen estas ayudas tampoco nos consuela pero por otra parte también quiero recordar que lanbide

porque dispone de dotación suficiente las ayudas que se dan desde la otra vertiente para el mismo fin es decir ayudas para que las empresas

para la conciliación de la vida laboral y familiar de sus empleados y empleadas la cantidad que lanbide dedica a este fin es inferior estamos hablando

millónes de euros tampoco es un consuelo tampoco es un consuelo pero sí da cuenta de nuestro compromiso en esta materia compromiso

a pesar del doloroso retraso en el pago de estas ayudas eskerrik asko aburto jauna

dice usted que no han desaparecido que se han agotado desde luego para las familias vascas que no las van a recibir las solicitadas a partir de febrero pues es como si hubieran desaparecido porque las van a cobrar

y los nuevos solicitantes cuándo las van a recibir y los solicitantes del año que viene tienen que esperar al siguiente por lo tanto yo creo que claramente las familias vascas dejan de contar

de pago no saben cuándo se les va a abonar o en el mejor de los casos con retraso por lo tanto el objetivo de la conciliación difícilmente creo que se pueda o que lo puedan mejor dicho cumplir cuando habla usted

que no son ampliables conceptos ampliables mire la renta de garantía de ingresos

complementaria de vivienda son ampliables porque viene la previsión en el punto trece de créditos ampliables

contemplados como tales también en el siguiente punto en el punto catorce casualidad que además en este listado van juntos por lo tanto estamos hablando de conceptos ampliables que son ampliables automáticamente hasta cubrir el gasto si no cómo ustedes hacen lo de la rgi por qué tienen esta previsión de créditos ampliables y esta el señor gatxagaetxebarria en la ley de presupuestos

con las ayudas a las familias es que además van seguidas o sea las prestaciones económicas previstas en la ley para la garantía de ingresos en la inclusión social son ampliables porque ustedes tienen esta previsión

por qué no lo hacen es una cuestión meramente de voluntad política claro y luego hay dinero para otras cosas para no sé cuantas campañas para criticar

en financiar medios afines hablamos de lo que quiera señor aburto me imagino que también cuanto sea candidato a alcalde también va a tener ocasión

que se hiciera eco de la realidad de la calle

que lamentan el retraso pero es que no se trata de retraso es que estamos hablando de ayudas para la conciliación

las personas que lo solicitan lo solicitan porque quieren conciliar su vida laboral y familiar luego parece ser que cuando habla de las mujeres

claro pues es que si estas mujeres si no tienen ayudas a la conciliación no van a poder

es que es un colectivo con especiales dificultades que si no cuentan con las ayudas pues va a tener y va a seguir teniendo dificultades para estar en el mercado de trabajo

no sé si usted con su intervención está planteando que al final son unas ayudas que perjudican a las mujeres porque no sé si ya

extraer esa conclusión mire yo la verdad es que en otras comunidades autónomas exactamente

cómo ha derivado este tema pero sí le puedo decir que ustedes deberían de estar especialmente preocupados

deberían estar con los índices de natalidad que tenemos

con la pérdida de población y desde luego estas ayudas

con otras muchas desde luego contribuir apaliar todos estos problemas estructurales

y en definitiva para concluir parece ser que no es propósito de este gobierno ampliar las ayudas a la conciliación aunque podrían hacerla porque es un crédito ampliable está dentro de los créditos ampliables en el punto número catorce igual que

siendo un crédito ampliable se puede automáticamente ampliar

perjudica a las familias y desde luego perjudica a un sector que deberían ustedes tenerlo como prioridad en la agenda política de este gobierno que son también las mujeres porque es un colectivo también afectado

no está como prioridad en este gobierno y que aquel eslogan de que las personas
son lo importante para este gobierno pues parece ser que ya a mitad de la legislatura o yo creo que antes se lo ha llevado el viento nada más muchas gracias eskerrik asko garrido andrea

mire señora garrido me hubiera gustado debatir hoy

sobre la campaña que ustedes han calificado de tendenciosa

porque lo realmente tendencioso y engañoso es utilizar las redes sociales para difundir una media verdad

si quieren para trabajar juntos en favor de la dignidad de las personas

quisiera trasladarles también que con este gobierno comprometido en mantener estas ayudas aunque con retrasos dolorosos

tener en cuenta los argumentos que he expuesto la cuantía de las ayudas la feminización de la conciliación no me interprete mal señora garrido no me interprete mal sabe de sobra lo que pienso sobre ese asunto no intente busque dentro de su partido realmente

en ese sentido y no las busque en mí contraste con las ayudas por hijos si entre todos iniciáramos un proceso de reflexión

que no debe afectar a este gobierno el problema de este país usted lo ha dicho es estructural y requiere una medida estructural para afrontar de verdad el problema del envejecimiento y va a requerir políticas

y esas señora garrido desde luego como no se van a hacer es bajando impuestos no se van a hacer bajando impuestos necesitamos

a que no soy yo quien está diciendo que hay que bajar impuestos sino a veces y quizás siendo políticamente no muy correcto estoy diciendo lo contrario

y de otras que hemos conocido este verano en los cursos que hemos realizado en la upv se nos apunta que no tiene efecto dar dinero para incentivar por el primer hijo

por contra parece que sí puede ser más determinante a la hora decidirse por tener el segundo en esa brecha

donde hay que hacer el esfuerzo en resumen y a modo de conclusión no hemos suprimido las ayudas usted lo sabe no hemos suprimido el decreto está en vigor estamos retrasando los pagos

las va a cobrar y no es un problema de voluntad política es un problema de carencia de recursos no vamos a gastar más de lo que tenemos y no hemos sido nosotros lo ha dicho el lehendakari en una de sus intervenciones quienes hemos modificado la constitución para contener el déficit de esa manera tan profunda digamos

el hecho de que aparezca como partida ampliable entre otras cosas puesto así

del gobierno lo único que quiere decir es que puede ser ampliable si hay recursos

usted sabe también como yo que eso es así y que sino hay recursos por mucho que se diga que es ampliable

sabe también que aunque no se diga se puede ampliar si hubiera recurso por lo tanto

sino de carencia de recursos por lo tanto termino no hemos suprimido las ayudas cumpliremos aunque nos retrasemos

diferentes que fomenten la natalidad en nuestro país lo que nos debiera llevar a una reflexión seria y en su caso a una modificación del cambio normativo que avale esa estrategia

no tienen desperdicio lo que ustedes dicen involución del estado de las autonomías

cercena la imagen institucional degrada la autonomía política pretende convertir a euskadi en mero agente auxiliar del poder central

no hemos visto un centralismo tan agresivo ni en tiempos del franquismo politika orokorreko plenoan lehendakariak berak ere kritikari

horrela erantzun zion quiroga andreari sobre la base de los principios

es una recentralización y en nuestro caso socavar el autogobierno vasco eta aitortu behar dut interesgarria dela

osoa ordainduko duela aceptan ustedes por la vía de los hechos el papel que ustedes mismos critican al informe cora el papel de mera sucursal de madrid

por lo tanto están de acuerdo con las políticas de recorte

vamos a ser firmes y rotundos qué quiere decir eso zer esan nahi du horrek

cora comisión para la racionalización administrativa

egokitu zuen horretarako horretarako jaso zuen dokumentuan esaten zuen a la vista de las modificaciones legislativas referentes a la edad de jubilación

intsumisiorik praktikatu procede adecuar

como máximo a la edad legal de jubilación del personal solicitante para acceder tanto a la jubilación anticipada

en el plazo de un mes anule el acto por el que se acordado el abono de dicha paga extraordinaria de conformidad con lo previsto en el artículo sesenta y cinco de la ley eta

sino que se ha explicado ante la plantilla a través de intranet la voluntad política de abonar dicha retribución

diferente y mejora de la eficiencia en la cuantía consignada en el anexo que se adjunta a este acuerdo

madrileko aginduari men es incompatible con el pago de la paga extraordinario declarado expresamente por la diputación beraz

manipulatu egiten dudala esaten du el objeto de la regulación propuesta se define en el artículo uno de la norma y es establecer el alcance de la singularidad foral

cómo determina dicha singularidad la aplicación de las medidas previstas

precisamente esta ley contiene tres cláusulas de especialidades para la comunidad autónoma del país vasco